muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor

un servidor ya tuvo ocasión en el debate de la enmienda de totalidad a este proyecto de ley de explicar algunos de los argumentos fundamentales que a su vez explicaban esa enmienda de totalidad

esta ley que definitivamente se aprobará por una mayoría de esta cámara son

no apoyaremos esta ley en ese debate producido en esta cámara hace tres semanas me

a explicar todo lo que tiene que ver con las razones procedimentales o temporales para la presentación de este proyecto de ley por parte del gobierno vasco dije en aquella ocasión que el proyecto de ley fue presentado con prisas y de manera precipitada

electorales y partidistas del partido en el gobierno el partido nacionalista vasco dije que llamaba la atención que tanto el gobierno vasco como el partido nacionalista vasco hubieran priorizado la aprobación a marchas forzadas de esta ley a otras que pudieran ser

la sociedad vasca como pudieran ser la ley de transparencia la ley del sector público la ley de empleo la ley de empleo público entre otras muchas que tendrían

en la vida de los ciudadanos vascos añadí también que la decisión del partido nacionalista vasco y de eh bildu de impedir la ampliación del plazo

solo podía entenderse como lo que pensamos que sigue siendo otra cacicada política protagonizada principalmente por el partido nacionalista vasco así decía se entregó a la cámara un trabajo a medio hacer un proyecto no lo suficientemente trabajado con un buen número

no resueltas que terminarán invalidando la ley todas las leyes deben ser jurídicamente seguras pero esta en concreto teniendo en cuenta su polémico contenido más que ninguna otra y ciertamente entender no lo es esto digamos que pueden ser argumentos menos importantes que otros que hacen que nosotros no vayamos a apoyar esta ley hay

jurídicos el primer obstáculo es su clara nota de inconstitucionalidad en lo que se refiere a su ámbito de aplicación es inaceptable que se pretenda reputar como víctima de abusos policiales o de violencia política a alguien sin el preceptivo juicio porque la potestad jurisdiccional que abarca la capacidad de juzgar

corresponde a jueces y magistrados de manera exclusiva

a través de procedimientos meramente administrativos o incluso en el caso de sentencias penales absolutorias estaremos validando normativamente la posibilidad de incumplir

igualmente en entredicho queda la presunción de inocencia de los eventuales victimarios así como el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos derechos fundamentales

de la constitución habría más problemas de inconstitucionalidad de aceptarse lo recogido en el proyecto de ley nos encontraríamos ante una clara vulneración del principio non bis in idem

así como de la prejudicialidad penal que da prioridad a los procedimientos penales en curso

administrativos y civiles cuando se esté juzgando hechos determinados por vía penal

esta ley quiero realizar algunas reflexiones políticas

y el terrorismo en el país vasco al tiempo se trata de aclarar torpemente nuestra opinión que no se puede interpretar

la violencia terrorista desde la óptica de la asunción de la existencia de abusos policiales cosa que por otro lado es evidente que bildu ha tratado de hacer históricamente trata de hacerlo a día de hoy y seguirá tratando de hacerlo en el futuro

opinión si se trata de hacer una ley para proteger a las víctimas de abusos policiales y a su vez se intenta contextualizarla en el marco histórico etarra habrá que acertar a contar la realidad de los hechos habrá que decir en primer lugar que la existencia de abusos policiales es una reprobable práctica minoritaria de malos profesionales que se excedieron en el uso de sus funciones y ejercieron comportamientos indignos

independientemente por cierto de que hubiera o no actividad terrorista independientemente de quien fuera la víctima de abusos policiales

hubieran podido producirse es decir en cualquier caso y lugar también fuera de la comunidad autónoma de euskadi estos casos son absolutamente

la violencia terrorista tiene una génesis y una naturaleza completamente distinta

a la víctima concreta de una determinada acción terrorista sino de elevar la malignidad del acto a una víctima superior y generalizada la sociedad

que han podido existir de equiparar de manera velada todo tipo de violencia porque la criminal excepcionalidad de la violencia terrorista radica en su impacto siempre ha perseguido condicionar la vida y la libertad

sino del conjunto de conciudadanos e instituciones democráticas que la rodean no digo que ello sea lo que claramente se pretende pero algo de eso hay

es esta cámara el lugar efectivamente necesario donde deben decirse estas cosas y quizás ningún otro grupo vaya a decir

lo primero que cabría es analizar el por qué se oculta para la gran tarea pendiente

vasca y también del conjunto de la sociedad española dignificar al conjunto de víctimas de la violencia predominante y hegemónica de los últimos cuarenta años en el país vasco

etarra deseamos recordar pero recordarlo todo puesto que entendemos que es la única manera de dignificar el presente y labrar un futuro

en euskadi el noventa y nueve por ciento de las víctimas de la sociedad vasca son las resultantes de un sostenido y constante

cometido por una banda criminal y totalitaria llamada eta en euskadi al contrario de lo que algunos se han empeñado erráticamente en señalar no ha faltado nunca sino libertad exactamente la libertad de la que se privó

a la mitad de la población aquella que no comulgaba con los postulados del pensamiento nacionalista por tanto

únicamente un grupo de fanáticos y totalitarios que con el apoyo de los servicios

trató durante décadas de sojuzgar las garantías democráticas y la convivencia

a todas y cada una de las víctimas que pueda haber de abusos policiales entendemos que es de justicia que todo abuso de los derechos humanos sea condenado repudiado perseguido

es imprescindible trazar con claridad la línea divisoria entre víctimas y victimarios no solo para garantizar la justa restitución de la dignidad de la víctima

retributiva al victimario sino también y de manera muy especial para no perder nunca el horizonte de dignidad que cimienta todo sistema democrático

es que hasta el más repudiable de los victimarios también ha de aplicarse las garantías jurídicas y legales que rigen nuestra convivencia pero entendemos como

en cuanto confunde el ámbito procedimental que ha de seguirse para que el legítimo fin de restituir a las víctimas se cumpla sin lesionar con ello ni los derechos fundamentales ni las garantías democráticas no es la administración vasca a quien le corresponde acometer juicios paralelos

esta posibilidad a espaldas de la única voz autorizada para juzgar hechos como los que pueden generar que alguien se convierta en víctima los juzgados y los tribunales

la potestad de orillar las funciones del poder judicial

a conveniencia la discrecionalidad de la administración por naturaleza y lógica siempre mayor que la del poder judicial nos plantea a su vez dudas sobre la neutralidad del procedimiento que se prevé si algo nos ha enseñado la experiencia nacionalista en estos años es que el carácter aséptico de la administración durante todos estos años de hegemonía nacionalista ha brillado por su ausencia

los gobiernos nacionalistas han tenido tendencia a favorecer a los de su cuerda es legítimo pensar que tamaña discrecionalidad de la administración vasca

del resto de administraciones del estado abre la veda al riesgo de que esta ley se politice en su aplicación como parcialmente también ocurre en su redacción no se puede aprobar una norma que desde su nacimiento aparezca con la tacha de perseguir

aparezca con la tacha de perseguir objetivos políticos sesgados con

de los cauces procedimientos correctos en definitiva estas son las razones que nos impiden apoyar esta ley que la mayoría de esta cámara en todo caso aprobará

gracias señora presidenta buenos días señorías lehendakari señoras y señores consejeros consejeras bien

inicialmente de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita ahora contextos de

reproducimos el debate en este último turno que ya se produjo también

comisión con una misma posición política recordamos que mi grupo presentó una enmienda de totalidad que también fue defendida en este pleno y está claro que para nosotros el planteamiento realizado en este momento sigue la actualidad nuestras enmiendas han pretendido no entrar en contextos

que se hubieran podido producir y que se puedan acreditar por actuaciones y resoluciones judiciales con

nuestras enmiendas han tratado de desbloquear algunas cuestiones no constitucionales pero lamentablemente no lo hemos conseguido mantenemos el criterio

en relación con dos cuestiones importantes la primera la tramitación exprés de un proyecto de estas características y la ausencia de un más sosegado más sostenido y de más posibilidad de análisis de muchas de estas cuestiones a regular se necesitaba más tiempo más sosiego para resolver muchas dudas jurídicas y estas dudas jurídicas por otro lado

alberga dosis importantes de inseguridad jurídica fundamentalmente

que fijan el objeto de la ley y el ámbito de aplicación de la misma esos conceptos motivación política en este

y es el contexto que preside el recorrido y el reconocimiento de toda la ley funcionario público con graves elementos de

en servicio o fuera de servicio medios de prueba en un procedimiento no judicial ni vinculado a uno previo necesariamente

y además como dijo el señor fernández el secretario general de paz y convivencia el pasado día catorce de julio fecha de la reunión única

el ámbito de aplicación del proyecto sigue siendo el mismo proyecto de ley eso lo dijo después de la salida de la reunión de la ponencia

él dijo que se mantiene el tronco fundamental lo lógico entonces es que nosotros mantengamos también ese criterio en relación con la enmienda de totalidad y

certidumbres de inseguridad jurídica palmaria fundamentamos nuestro rechazo a la ley al proyecto de ley en este caso en la indeterminación jurídica del mismo en la incertidumbre interpretativa del texto además

de deslindar importantes cuestiones competenciales sobre todo las del orden judicial cómo se demuestra en este texto legal

motivación política cómo se declara un contexto de motivación política qué proceso aparte de jurídico es decir que proceso político se establece para esa valoración cómo se declara un contexto delictivo de motivación política sino es por un juez es

determinación de daños el pericial etcétera ese no puede ser un proceso político se podría pensar que previa a esa aplicación de la ley debería de haber algún tipo de comisión política de análisis político de la situación referida desde luego algo extremadamente complejo puesto que eso ya lo hacen los jueces y nos centramos en el aspecto y en lo que regula

la futura ley fundamentalmente el ámbito de aplicación y eso es lo que no está desde nuestro punto de vista bien atado jurídicamente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

que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política es decir además de reiterativo es decir además de que no se explica eso queda absolutamente

que haya sido llevado a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de motivación política y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público

o bien particular etcétera etcétera es decir una cuestión extremadamente complicada y compleja que queda simplemente negro sobre blanco en un segundo apartado de una ley tan

y por otro lado la vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa o subsidiariamente en su defecto por cualquier medio de prueba admisible

sin que sea preciso que exista un proceso judicial previo es decir estas cuestiones

cerradas jurídicamente en esta ley estas cuestiones van a traer muchos problemas algunos parece que

que quiere que haya problemas en relación con la interpretación jurídica pero es que este texto su objeto y su ámbito de aplicación no está cerrado jurídicamente y mucho menos

en la votación pero jurídicamente no está cerrado y va a causar muchos problemas la propia cojua ya ha advertido sobre ello no hay más que leer el informe de la cojua

estamos transitando bien mi grupo presentó cuarenta y dos enmiendas

hemos retirado en el debate doce por haberse producido

a los artículos uno y dos y entonces dejaban de tener coherencia sistemática con el texto que nosotros pretendíamos entendemos

que lógicamente tenemos que decir una vez más ya lo dijimos en el debate de la enmienda de totalidad se hubiese necesitado más tiempo hubiese sido bueno hubiese sido sano más tiempo para debatir esta ley

seguramente que hubiesemos acertado hubiesemos mejorado esa seguridad jurídica que nosotros tenemos en entredicho y efectivamente como decíamos hemos tratado con algunas de nuestras enmiendas que ha sido aceptada a contribuir técnicamente a reenfocar alguna cuestión

lo que sí que queríamos y ya lo he explicado era un cambio radical en la concepción de la vulneración de los derechos humanos

sin aludir a contextos y eso esa cuestión no se ha producido en relación con el corto del poco debate inexistente debate parlamentario que se ha realizado en relación con este proyecto de ley de la misma manera que nos

la posible impugnación de una ley de estas características como

en relación con algunas otras referencias normativas precedentes

políticamente no es bueno jurídicamente y todas esas cuestiones bien se podían haber neutralizado vuelvo a decir en un debate más sosegado que hubiese incidido más en las cuestiones de seguridad jurídica en esos aspectos que les he dicho antes en relación con la motivación política con los funcionarios con los medios de prueba que están absolutamente sin atar

en un texto jurídico de estas características y que reconoce y que pretende reconocer derechos

un déficit importante de seguridad jurídica y ese es el elemento fundamental que nos hace votar

debatir de verdad sobre estas cuestiones pero se ha impedido ese debate

de valoración que a la vista de estos artículos uno y dos va a tener que hacer un papel muy complicado un papel muy complejo va a tener que hacer un papel el papel pericial el papel

de las cuestiones que supuestamente describe el ámbito de aplicación pero va a tener que hacer un papel que no le va a corresponder porque va a tener que hacer un papel jurídico y político

a esta comisión de valoración y ciertamente encontramos

de los artículos uno y dos desde luego encontramos una falta de acomodo legal y una profunda indeterminación señora presidenta estas son las razones que nos llevan
a posicionarnos en contra del presente proyecto de ley muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

nos implicamos en tramitar una ley sobre la que ya antes de nacer incluso se cernía la amenaza cursada quien habitualmente materializa las amenazas es decir por el ministerio del interior presuntamente no tenemos derecho de reconocer

nos implicamos en una ley que finalmente no se ha traído por medio del acuerdo no del debate no de la discusión sino por medio de un

porque no ha buscado en ningún momento la incorporación de eh bildu consideramos que durante este proceso hoy ya en su última etapa se han mostrado

en torno a las víctimas del estado primero la posición de pp upyd la posición de la negación no existen víctimas del estado

esta teoría o que contradiga este relato dos el modelo

pero que es un paso corto un paso dubitativo un paso tímido un paso al que no sabemos si seguirá otro ya que ahora tras el acuerdo realizado se ha retirado aquella previsión de continuidad

un paso al que solo seguirá otro dependiendo de la conveniencia o el calculo que haga el pnv dependiendo

resuelva sus contradicciones con respecto a la violencia del estado un paso que lamentablemente nos condena

de reconocimiento de verdad en varias décadas o si se culmina antes sea para cerrarlo en falso el modelo de eh bildu por último

integral para la verdad dicho de otra manera si se prefiere una comisión de la verdad de toda la verdad sin ambages a las claras es lo que queremos y es lo que dibujábamos además con las ochenta y tres enmiendas que presentamos una comisión de la verdad que acoja a todas las víctimas

sin plazos y sin requisitos en el debate de la

como modo de reproche que nosotros queríamos hacer una comisión de la verdad no me lo tomo como un reproche

es este nuestro objetivo debía de decir que tal vez fue el objetivo compartido por otros ya que este mismo parlamento aprobó

a crear comisiones de la verdad algo que entonces era el camino y algo que interpretamos hoy sigue siendo el camino guk gure

esas que pretendían blindar el proyecto en seguridad jurídica internacional esas que pretendían responder

esas que establecían mecanismos rigurosos de investigación esas que pretendían dotarnos de instrumentos para acompañar para caminar junto a las víctimas

tan solo tres han sido aceptadas tal vez valía más la pena asegurarse la mayoría con el partido socialista o tal vez acercarse al que amenazaba

de ahí se puede entender que de las cuarenta y dos enmiendas del pp se han llegado a aceptar treinta y uno está claro a quién se quería incorporar y a quién arrinconar pensamos que esta ley condena a las víctimas a seguir luchando a seguir peleando para que todas quepan en una ley integral igualitaria de verdad y justicia total eh bildu quiere completar este proceso

y facilitarles su camino cierto admitimos que con esta ley

reconocidas y reparadas que para algunas víctimas esta ley es una expectativa real de verdad y reparación porque no tenían ninguna expectativa

tal vez se abre hoy no una ventana pero sí una rendija

a que se dé este paso menos aún cuando se quiere poner en entredicho nuestra capacidad para reconocer para reparar como sociedad como pueblo a nuestras víctimas es por eso que nuestro voto hoy

abstención que viene acompañada de un compromiso el de seguir trabajando hasta satisfacer todos los derechos de todas las víctimas

en los últimos años con bastante acierto

una gran causa general en la que puedan diluir las responsabilidades propias en lo sucedido en estos últimos años y en ese camino no podemos acompañarles

del pp ha sido de distinto signo pero maximalismo al fin y al cabo el pp se ha enrocado en un lamento interminable sobre la tramitación exprés de la ley

ha pretendido oculta su falta real de voluntad política tras la pretendida falta de tiempo precisamente

alcanzado con el partido socialista de euskadi ha demostrado que además de conveniente era posible en tiempo y forma este acuerdo

la falta de voluntad política la falta de valentía y la falta de criterio propio del partido popular vasco frente al gobierno español hoy queda demostrado que quienes hemos querido de verdad

hoy queda demostrado que el partido popular no ha querido de verdad alcanzar un acuerdo el partido popular se ha quedado solo o mal acompañado

sigue hablando de dosis importantes de inseguridad jurídica desoyendo las opiniones de todos los expertos juristas que han valorado el proyecto de ley en comisión y cuando digo todos son todos incluidos los expertos convocados por el propio partido popular

por ejemplo el fiscal superior del país vasco ambos han afirmado con rotundidad que la ley es necesaria que la ley es irreprochable desde el punto de vista jurídico y que no encuentran razones que justifiquen una impugnación de la misma

no han querido hacerlo pero la realidad es incontestable la ley ofrece seguridad jurídica esto es lo importante es importante también dejar constancia del sincero esfuerzo del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi por incorporar al partido popular al acuerdo se han admitido

de las cuarenta y dos enmiendas presentadas por el partido popular no parece haber sido suficiente insisten en eliminar cualquier referencia al contexto victimológico en el debate en ponencia se ha eliminado la referencia la represión ilícita

tanto al partido popular como al partido socialista y se ha vuelto al concepto de violencia de motivación política

en nuestra opinión no mejora el texto pero ha servido hasta ahora y concita mayor contexto razón suficiente por tanto para aceptarlo ahora bien

no tiene ningún sentido su propuesta no aporta mayor seguridad jurídica todo lo contrario se lo explico otra vez aprobar una ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y punto como ustedes plantean

una caja de pandora de gestión imposible y de alcance presupuestario infinito

así sin más acotaciones ni contextualizaciones son todas aquellas víctimas de cualquier delito contra la vida la integridad física la libertad de movimiento de pensamiento la libertad sexual etcétera

las víctimas de la mayoría de delitos y faltas del código penal es imprescindible contextualizar y acotar el término no hacerlo es en realidad una forma de no hacer nada quiero recordarle además que el significado del contexto de motivación política es anterior a esta ley

de hecho la tramitación del decreto se asienta precisamente en el concepto de violencia de motivación política este concepto permite diferenciar radicalmente esta figura de la del terrorismo para así

de esto es precisamente de lo que estamos hablando señor barrio no de otras violencias

lo que les da miedo a ustedes usted se pregunta cómo

pero si ya se ha hecho se ha hecho en casi doscientos casos a los que se ha reconocido y reparado a través del decreto anterior no quieren ustedes reconocer la evidencia

porque la sociedad vasca y la consolidación de la paz y la convivencia así nos lo demanda a todos

politikak termino con una mirada a las auténticas protagonistas a las víctimas hoy un número importante de víctimas de violaciones de derechos humanos por abusos policiales o parapoliciales

verán abierto un camino para avanzar en sus derechos a la verdad la justicia y la reparación

sabemos y saben que es un paso más en un proceso necesario e inaplazable y que será gradual o no será otras ciento ochenta y siete víctimas encontraron antes su camino a través de decreto ciento siete barra dos mil doce por eso quiero hoy reconocer la dedicación y el cariño de quienes han contribuido a abrir caminos a las víctimas reconocer a las personas que lo han hecho posible desde la comisión de valoración carlos martín beristain

con marian sánchez como secretaria técnica su experiencia y el rigor del trabajo realizado van a ser fundamentales para continuar en este camino de verdad justicia y reparación a las víctimas
que hoy renovamos con la aprobación de esta ley eskerrik asko borondate bera dugu

que podríamos haber avanzado más podríamos haber cerrado acuerdos podíamos haber analizado esas dudas jurídicas que usted descalifica pero que yo le he planteado en mi primera intervención si hubiesemos trabajado en serio en una ponencia pues

con qué plazos de presentación de enmiendas con qué tiempo de

aquí no ha sido posible o sea que usted por lo menos acepte que yo pueda criticarles a ustedes la cerrazón

incapacidad de haber debatido el hecho de que hayamos podido poner sobre la mesa con más tiempo más argumentos jurídicos y más puntos de encuentro

de la que usted habla en relación con nuestra posición es la suya señor iturrate la de haber impedido un debate más sostenido más sosegado como el que yo le he exigido ya ha visto que yo políticamente en la ley no me he metido en el fondo del asunto salvo en las cuestiones

señor iturrate que hay una táctica no sincera en su posición con riesgos importantes y sin garantías suficientes en lo que es la consecución de esa táctica me da la impresión de que poco les importa

que no lo han trabajado suficientemente de que no señor no ha habido un pragmatismo sí que ha habido un maximalismo intelectual en relación con este tema cerrar un acuerdo cuanto antes aunque no sea normalmente

parlamentariamente debatido en una comisión en una ponencia en relación con buscar puntos de

que los grupos parlamentarios las posibilidades de fricción ponemos sobre la mesa que son dudas jurídicas y en ese caso dudas políticas parlamentarias que podemos desbloquear y que estábamos dispuestos a trabajar por ahí esa posición señor iturrate no es constructiva

las mejores leyes posibles y las que mejor se adecúen eso es lo que buscábamos nosotros en relación con este tema nuestra posición tenía que haber sido y es abrir un debate realista y proporcionado

claro nosotros hemos dicho que no nos gustaba o que entendíamos complicación en hablar de contextos antes de represión lícita o de violencia de motivación política del complicado tema de los funcionarios aseguraba

y desde luego nosotros en nuestras enmiendas y en nuestra posición era fijarnos

de debate que se hace en las leyes porque luego se llega a acuerdos se retiran enmiendas se llegan a transacciones el no contextualizar

de planteamiento inicial de debate parlamentario que usted bien conoce o sea que en ese sentido

que seguramente se confirmará con el tiempo en relación con los problemas que va a generar la aplicación de esta ley y pensamos

en relación con su posición sí que ha sido un maximalismo en relación

de haber procedido en relación con este planteamiento y yo le decía la primera vez finge la explicación de la motivación política

dos ámbito de aplicación de la ley en su punto dos dice lo siguiente a los efectos de esta ley se considerará vulneración de derechos humanos producida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

que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política

eso es una explicación no señor iturrate eso no es una explicación lamentablemente

la podríamos discutir pero eso no es una explicación jurídica ni política eso es un error

de planteamiento y de redacción en relación con esta ley pero eso no es una explicación y como eso lo demás

me gustaría que también leyesen y examinasen lo que la propia comisión jurídica asesora que les asesora a ustedes ha hecho en relación con esta cuestión en relación con los contextos en relación con algo tan importante y lo dice la cojua en cuanto a la posible conculcación del artículo ciento cuarenta y nueve punto uno punto veintinueve de la constitución española que atribuye al estado la competencia

pública por alusión a los funcionarios principalmente los cuerpos y fuerzas de seguridad

es cierto que la redacción del artículo dos punto dos contiene

de indudable calado entre ellos contexto de violencia de motivación política cuya reconducción al caso concreto presentará dificultades interpretativas lo dice la propia cojua señor iturrate en cualquier caso

constructivo de inicio en relación con esta ley se ha impedido el debate se ha impedido el análisis sosegado el tiempo el debate sostenido y eso nos llevará a votar en contra de este proyecto de ley en cualquier caso quiero desearles a todos un feliz verano

que es decir que no se están deslindando estas cuestiones de las que competen a la administración de justicia y que esto genera inseguridad y genera incertidumbre es una

impunidad y no es algo que diga yo sino es algo que dice europa en ocho ocasiones diciendo que españa la justicia española no investiga

desde el punto de vista de la igualdad porque me imagino que cuando otras leyes

a otras víctimas esta precaución no existía es decir ustedes sostienen una y otra vez que quedan trescientos cincuenta casos sin juzgar casos referentes

que no han tenido una sentencia judicial no se les ha dado una reparación por vía de las leyes de víctimas del terrorismo han quedado excluidas si en ese caso no han quedado excluidas por qué en este caso se produce esta exclusión que ustedes auguran yo creo que ustedes parten de una premisa

es la real y la certera y creo que lo dijo aquí en este mismo atril el señor antonio basagoiti hace ya unos años

eta ha generado ochocientos cincuenta asesinatos y los que estamos a favor de la unidad de españa hemos generado cero cero eso no es una cuestión de fallo aritmético esa no es una cuestión de fallo de contabilidad eso es cuestión de querer imponer un relato un relato

profundicemos en la verdad y en la realidad ese relato cada vez va a quedar más en entredicho iturrate jaunak esaten zidan

esta ley ante el recurso del estado ha sido rebajar las expectativas de las víctimas y retocar

y para mejorarles la digestión al tribunal

al respecto nos habla de continuidad de que esto es un paso pero que tendrá otros pasos

retirar el apartado que tiene esta literalidad que el periodo de cobertura se extienda hasta el año mil novecientos noventa y nueve no prejuzga que con fecha posterior dejen de existir hechos constitutivos de vulneraciones de derechos humanos de motivación política que deberían en su caso ser objetos de atención de futuras iniciativas que den continuidad a esta regulación porqué ustedes

original que incluso el señor lehendakari lo puso en valor

que van a aprobar me menciona y me hace una comparativa con la

y le quiero decir que es que no es la misma situación en

una competencia legislativa del ámbito penal y por lo tanto estamos sometidos

que la legislación española hace de la eutanasia sin embargo con esta ley ejercer la memoria todavía no está tipificado como delito

el camino que lleva el pp vista la actitud que tiene con esta materia niego que haya un problema competencial aunque se invoque para intentar bloquear por otros motivos como digo y con otros objetivos esta ley ustedes me dicen que esta es una

pero creo que se establece sobre un terreno pantanoso que establece víctimas fuera y que establece la diferencia entre víctimas

porque hablo de una comisión de la verdad usted apoyó aquella proposición no de ley del veintiocho de noviembre del dos mil ocho que hablaba de establecer comisiones de la verdad no soy yo el que fallo a una posición más prudente sino que es usted tal vez el que está faltando a la palabra que dio con su voto a aquella proposición

ese es el camino y en todo caso es el camino que nos estamos marcando y ese es el objetivo y precisamente por eso ante el paso que reconozco hoy se da corto dubitativo tímido por eso nos vamos a abstener

izan da jarrerak argiak eta ezagunak aurretiaz por qué retirar la voluntad de

la voluntad de continuar el proceso pues la respuesta está en las palabras de la señora ubera

y en fin es que claro la

la que ha quedado desmentida en la intervención del señor barrio o en el informe del ministerio del interior señor barrio

y la voluntad de incorporar sus enmiendas a la ley desmiente la cerrazón y la voluntad

a dar ese paso que les demanda la sociedad y que algún día tendrán que dar la ley incorpora todas las objeciones y todas las sugerencias que

hizo mire el señor presidente del tribunal superior de justicia del país vasco al que usted trajo a comparecer dijo

no he visto ningún elemento de inseguridad jurídica en este proyecto de ley no tengo nada más que añadir en este debate respecto a la inseguridad jurídica nik uste dut

variación de esa máxima española dice dos no acuerdan si uno no quiere y hemos logrado

de esta legislatura y muy diversos con muy diferentes grupos políticos por lo tanto

la participación en los acuerdos muchas gracias también desde el grupo nacionalista eta batez ere nire taldeari gogor eta gogoz egin duzuelako lan

los socialistas tenemos la convicción de la necesidad de reparar las diferentes vulneraciones de derechos humanos que se han padecido en este país por eso hoy hemos respaldado

igual también que lo hicimos con la ley de víctimas del terrorismo que repara a las víctimas del terrorismo ilegítimo de eta y las del terrorismo ilegítimo de quienes quisieron

inadmisibles armas y lo hicimos también con el decreto que reconoce a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante el franquismo porque hubo quien se valió de la excusa de eta para abusar de su poder y provocar sufrimientos

y es lo que hacemos ahora cuando asumimos en el ámbito de nuestras competencias el mandato constitucional de amparar a quienes en democracia se hayan sentido desamparados en sus derechos

es el principio del camino lo dije cuando aprobé aquel decreto y lo repito hoy que aprobamos esta ley es un camino que iniciamos

pero las prisas han impedido tejer consensos más amplios y ahora le corresponde a este gobierno garantizar que los reconocimientos que prevé esta ley

del reglamento que queda pendiente de elaborar y esto es lo que hemos acordado para que la ley no sea objetable en los tribunales de justicia

de seguir dando pasos seguros y de seguir tejiendo consensos horregatik eskatzen diogu berriro ere lehendakariari hurrengo urratsak ziurrak

biktimentzat onuragarria izan behar du legeak y a ellas precisamente me quiero dirigir a quienes sufrieron injustamente por abusos de poder excesos policiales o por indefensión por las denuncias presentadas

y les despojaron de toda dignidad y todo derecho pero también quiero decir que fueron funcionarios minoritarios porque en democracia

han sido respetuosos con el estado de derecho porque la labor de esa gran mayoría de servidores públicos fue imprescindible

y también con las bandas que utilizaron a eta como excusa para sus crímenes y la ley solo mira a las víctimas como dice ella sin ninguna otra interpretación posible y así queda claro definido en el texto

es importante y otras sin embargo que se queda corto pero hay un claro compromiso

la reparación de quienes hayan visto vulnerados sus derechos los socialistas hemos hecho exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer

lo hice para que no se perdiera toda la legislatura en la que se han debilitado mucho

sin ser capaces de alcanzar ninguno nuevo ningún intento voluntarioso ni mediático ha conseguido en esta legislatura cambiar la actitud de quien es incapaz de decir

porque al margen del sentido de voto que se ha visto en esta cámara hoy yo sé que todos y cada uno de los que nos sentamos en estos asientos los setenta y cinco asumimos

pudo abusar de su poder que jamás ninguna persona debió ser torturada amenazada secuestrada o asesinada por ninguna razón o excusa de estado pero hoy

amenazado secuestrado o asesinado por el proyecto político que quiso imponer eta por eso aprobamos esta ley pensando en que sea útil a quienes han sufrido injustamente y han estado olvidados durante muchos años pero en relación a la convivencia estamos como hace cinco años

y tendremos que reflexionar sobre ello la próxima legislatura deberemos recuperar ese mínimo ético tan simple que dice que matar siempre estuvo mal

sozialistak izan gara denetan sozialisten ahalegin berarekin y yo le pido lehendakari que aplique con intensidad

sea seguro porque una guerra de informes y recursos no va a reparar a las víctimas los socialistas queremos seguir construyendo la convivencia con todos los que compartan sin disfrazar las palabras que matar estuvo siempre mal

compartidos dentro de euskadi y compartidos también con el gobierno de españa porque esos consensos nos permitieron derrotar a eta

desde la memoria la reparación la deslegitimación ética social y política de la eliminación del diferente con el único objetivo de conseguir objetivos políticos esa es la vacuna contra cualquier tentación de violación de derechos humanos y esa base ética junto con la igualdad y la solidaridad es la que nos va a permitir construir sociedades decentes

llegamos con la satisfacción de haber escuchado a todas las personas interesadas como es lógico

sugerencias alegaciones lo que no hace necesariamente peor esta ley

de que el texto que hoy se va a debatir que hoy va a pasar por el ultimo trámite

con garantía de seguridad jurídica y además protege a usuarios y al sector por igual en ciento diez artículos organizados en siete títulos

y conseguir que la industria turística de este país sea más competitiva atendiendo también

lo más destacable de esta ley para este gobierno son tres conceptos análisis participación

la oferta alojativa de este país debe quedar claro que el gobierno vasco ha escuchado durante dos años la petición del sector de regular esta oferta y ha analizado contrastado y buscado el consenso para hacerlo de la mejor forma en este sentido es una ley aperturista

negocio como actividad turística pero además establece las condiciones para hacerlo

gracias a esta ley será una realidad la regulación de las viviendas para uso turístico así como el alquiler de habitaciones en viviendas de uso turístico también

contempla las siguientes figuras establecimientos hoteleros apartamentos turísticos campings agroturismos y casas rurales

otros tipos es un capítulo que habrá que desarrollar después en los decretos y viviendas para uso turístico y alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para el mismo uso

a la necesidad de desarrollar un plan territorial sectorial turístico así como planes directores de destino estas herramientas definirán después con detalle

y porqué y sobre todo cómo ordenar el mapa turístico vasco el capítulo cuarto de la ley hace referencia a los derechos y deberes de las personas usuarias turísticas este apartado supone un gran avance reconocido por organizaciones de consumidores presentes en la redacción de la presente ley y que lo han calificado como modélico por el nivel de protección de quienes en condición tanto de turista como de residente conviven

es de personas consumidoras con derechos pero también con deberes reconocidos siguiendo estándares europeos los más exigentes que se pueden alcanzar y que están recogidos en este texto además la ley reconoce empresas de interés turístico es decir no es competencia de esta ley regular esas empresas pero sí reconocer actividades que aporten claro valor en el ámbito turístico

de actividad económica real en la que actúan empresas que dan servicio a los y las turistas a los y las viajeras que nos visitan en diversos ámbitos tales como el transporte

considerando nuevos usos y costumbres que se están dando creando nuevas figuras que hasta ahora no se habían considerado y protegiendo la actividad tanto de las empresas como de las personas viajeras que nos visitan sin olvidar evidentemente a los que vivimos y trabajamos todos los días aquí

que aconsejan una concreción normativa específica de la que emane evidentemente una producción normativa de desarrollo en un marco jurídico general y homogéneo

sabemos que el sector turístico necesita y espera esta ley

muchas horas de análisis y de trabajo de trabajo conjunto y de consenso real que entre otras cosas permite que la regulación de las viviendas para uso turístico y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico quede recogida permite a su vez una categorización basada en infraestructuras y servicios prestados la adecuación de la norma a nuevas formas de comercialización a través de internet la inclusión del principio de unidad de explotación que permite

la inclusión expresa de la exigencia del cumplimiento de la normativa medioambiental y la integración de la sostenibilidad y quiero detenerme un momento en este punto el texto señala y sella definitivamente la apuesta por el turismo sostenible que el gobierno vasco viene trabajando desde el año dos mil ocho con la participación en el proyecto europeo para desarrollar el marco de coordinación entre programas regionales de investigación e innovación en turismo sostenible

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señores parlamentarios nos encontramos en el debate del proyecto de ley de turismo un proyecto reiteradamente demandado por el sector

ha tenido varias legislaturas se ha tomado dos años para la redacción de este proyecto seis meses para contestar las alegaciones un año

de tal manera que llega a esta cámara en el último minuto del final del partido si no

ahora otra ley que nos acaba de traer el gobierno porque el gobierno manejaba otros intereses como prioritarios no eran estos sus intereses por lo tanto hablemos claro

atender la reivindicaciones de los diferentes agentes sectoriales y realizar las oportunas enmiendas la mesa de la cámara no ha defendido los derechos de los parlamentarios la mesa ha priorizado los intereses del gobierno por encima de los derechos de los parlamentarios no debe ser este el papel de la mesa en el grupo popular no nos asusta el trabajo

para mejorar como es este caso las nuevas oportunidades de negocio que se plantean en el sector del turismo pero también demandamos respeto cumplimiento del reglamento se nos informó por parte del gobierno que el texto aprobado tenía pleno acuerdo sectorial nunca más lejos de la realidad lo que quedó demostrado en las comparecencias es que el sector estaba de acuerdo avanzar en la tramitación pero que el texto era sustancialmente mejorable nos lo expusieron muy claro y expusieron sus demandas y mejoras por cierto demandas muy razonables y que desde el grupo popular

con el aprecio del acuerdo pnv bildu el tándem formado para la aprobación de esta ley desde luego siendo todas muy importante no son las más determinantes

de proceder del gobierno en la tramitación de este proyecto con presiones fuera de lugar en todo caso y sin entrar en pormenores trato modos y maneras mejorables decir que para el grupo popular el proyecto de ley de turismo que entró en esta cámara

hecho mirando el retrovisor pensando más en modelos de turismo del siglo pasado e intentando sortear las nuevas realidades y actividades turísticas que hoy son elegidas mayoritariamente por los consumidores un proyecto de ley

en el texto y en los modos efectivamente han transcurrido más de veinte años desde la aprobación de la ley

en estos más de veinte años se hizo una actualización

incluyendo algunos términos nuevos figuras alojativas nuevas como eran las casas rurales pero curiosamente se eliminaron otras como eran las viviendas turísticas

que estaban conectando a personas con sitio libre en su hogar con viajeros que buscaban

ya estaban recogidas en la ley del año noventa y cuatro pero se eliminaron se

y hoy se vuelven a incorporar a este nuevo proyecto desde el grupo popular coincidimos plenamente con los agentes sectoriales de turismo en la necesidad de una nueva ley que recoja la regulación del sector turístico actual el sector turístico es uno de los sectores más afectados por las nuevas tendencias que se imponen a partir de la globalización del mercado

por lo que no resulta práctico ni efectivo dar la espalda a las nuevas tendencias del sector que se han impuesto en europa en estado unidos referidas principalmente al uso del alojamiento privado

que han llegado para quedarse el proyecto de ley que llegó al parlamento no resolvía la necesaria regulación de las figuras de viviendas turísticas

de manera que facilitase su actividad y que recoja las características específicas de cada una de ellas decir

vacacional y el consumo colaborativo el alojamiento de residencia habitual distintos aunque en algunos casos puedan tener puntos de conexión en las viviendas de uso turístico creemos que el trabajo de ponencia ha resuelto de manera satisfactoria

desde el grupo popular entendemos que el alojamiento en residencia habitual no debe incluirse en la normativa turística debiendo mantenerse en el ámbito de aplicación de las normas del derecho civil

en este sentido mantenemos vivas varias de nuestras enmiendas que entendemos

al artículo uno del objeto de la ley porque es curioso que

en este nuevo proyecto de ley se ha eliminado o se ha incluido la palabra disciplina algo que no estaba en la ley del año noventa y cuatro

el objeto de la ley debe ser la regulación de la actividad de euskadi así como el establecimiento de los principios y criterios de actuación de las administraciones turísticas y eliminar la disciplina porque creemos que implica subordinación entre los miembros de una actividad hecho que no procede del objeto de la ley del turismo nos parece

en ningún objeto de ninguna ley de turismo de

las comunidades autónomas por lo tanto es que no entendemos

concepto tan fuera de contexto en el objeto de la ley

enmiendas encaminadas a garantizar la accesibilidad universal a todos los servicios y recursos turísticos algunas no han sido

principalmente artículos tres y veintisiete dice el proyecto de ley que la competencia desleal será objeto de control y sanción por parte de las autoridades administrativas esto

cuyo objetivo es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado esta actividad u otra tenemos una normativa

incluida la publicidad ilícita en los términos de la ley general de publicidad la ley de competencia desleal contiene prohibiciones muy concretas y detalla las actividades que se reputan actos de competencia desleal así como las acciones judiciales que se pueden ejercitar como secuencia

el intrusismo es un delito tipificado en el artículo cuatrocientos tres del código penal en lo referente a las viviendas de uso turístico alquiler de viviendas

en el lugar visible desde el exterior los símbolos acreditativos de su clasificación nos parece una exigencia que puede confrontar con las normas de las comunidades de vecinos y limitar la libre competencia además de frenar la entrada en el mercado de actividades turísticas

en la calidad del servicio por lo tanto no consideramos apropiado

mantenemos las enmiendas al artículo cincuenta y tres punto uno y al artículo cincuenta y cuatro especialmente

y desde el grupo popular entendemos que la regulación que debe regir este tipo de alojamientos es la ley de arrendamientos urbanos y en su caso el código civil como ya he dicho antes

burocracias trabas burocráticas e injustificadas e innecesarias que en muchos casos frena la puesta en marcha de actividades turísticas señorías tenemos en trámite una norma que podíamos llamar una norma en blanco de la que se derivan

multitud de desarrollo reglamentarios pero se derivan desde textos

lugar a muchas interpretaciones y muchos desarrollos por lo tanto no compartimos

prácticamente en blanco también hemos hecho unas enmiendas a la tipificación de las infracciones porque entendemos que debe ser proporcional al volumen de actividad además puede resultar

una sanción económica para una actividad que tiene un volumen económico de diez mil euros al año que para una actividad económica que tiene

que esto debería estar contemplado en la ley decir que entendemos desde el grupo popular que se ha perdido la oportunidad de hacer una ley para el sector turístico que mire al futuro

ni el grupo que apoya al gobierno ni eh bildu como grupo elegido para aprobar esta ley

hablan de construir un modelo turístico propio de emprender un camino propio vuelta a la matraca propio a ver estamos hablando del sector turístico el cliente que accede a nuestro mercado

entiende de turismo propio entiende de valores turísticos que se ponen en conocimiento ya

desde el grupo popular apostamos por un sector turístico que esté en la vanguardia

con su correspondiente regulación y oportuna cobertura reglamentaria pero en definitiva propiciar nuevas vías a la inversión y a la creación de dadas empresas

de trámites que en definitiva contribuyan a la reactivación de la actividad económica y en consecuencia a la creación de empleo además de dar solución a una parte del sector inmobiliario y para cerrar quien solo aspira a blindarse

acaba ahogado por el progreso nada más muchas gracias

sí gracias presidenta consejera consejero

en primer lugar a todos los agentes del sector que han venido hoy a esta cámara y a los representantes institucionales de la diputación foral de gipuzkoa y de la diputación foral de álava gracias por asistir a esta sesión desde el grupo socialista vamos a defender en este primer turno las enmiendas que hemos reservado para el pleno

a petición del grupo socialista para conocer los asuntos pendientes de incorporar a la ley y para su necesaria mejora presentamos setenta y siete enmiendas de las que se han logrado asumir y transar treinta y tres treinta y tres enmiendas socialistas con las que hemos mejorado el proyecto de ley

con la incorporación de los principios de cohesión territorial y social

con el tipo y calidad del empleo a promover y con algunos asuntos sobre accesibilidad

establecimiento y con la aclaración determinación y respeto de las competencias de las diversas administraciones vascas entre otras aportaciones socialistas

en aquellos asuntos que consideramos que son más importantes y que van a justificar nuestro voto contrario a algunos de los artículos de la ley porque además de no resolver

plantean inseguridad jurídica en el desarrollo de ciertas empresas turísticas y además algunas incorporaciones realizadas con motivos de pactos de última hora

los socialistas vascos pensamos que el gobierno vasco ha perdido una gran oportunidad para abordar asuntos de calado estratégico para el futuro del turismo en euskadi y esa oportunidad perdida

cuando teniendo competencias propias y exclusivas el gobierno vasco pierde el tren y la posibilidad de situar a euskadi en cabeza de la modernidad turística porque miren no se ha aceptado muchas de las propuestas que se planteaban por ejemplo

por asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica en euskadi cuando lo único que pretendían era avanzar con determinación

los socialistas insistimos también en la necesidad de crear por ley un órgano interinstitucional en euskadi un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento además de la actual mesa de turismo esta iniciativa se ha encontrado con el no rotundo de un pacto entre bildu y el pnv

igualmente aprobada el ocho de junio en las juntas generales de gipuzkoa con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del partido nacionalista vasco que decía se cree un órgano a nivel de euskadi que promueva un reparto equilibrado del turismo de congresos en el que existen desequilibrios entre territorios capitales y comarcas las respuestas y las excusas del gobierno a través del partido nacionalista vasco han sido variopintas que ya hay bastantes órganos que se trata de una cuestión competencial que no se pueden comparar congresos con reuniones de trabajo que el estudio realizado en su día es cuestionable etcétera

nos dice que crear este órgano solo para el reparto de congresos es un exceso y ahora va a resultar que bildu en gipuzkoa es un partido de excesos o que no se tiene la misma sensibilidad y se ven las cosas desde un territorio como bizkaia

de los eventos que organiza el gobierno vasco a cómo se ven las cosas desde territorios como álava o gipuzkoa con solo el veintiséis coma ocho por ciento de los congresos

que suponen los congresos privados seguimos de verdad sin comprender la actitud incoherente de bildu en el asunto del turismo de congresos porque pone en cuestión

cuando estaba gestionando por bildu y además da la espalda a un amplio acuerdo del que bildu fue partícipe

como decía a excepción del partido nacionalista vasco los socialistas estamos convencidos que el pacto entre bildu y partido nacionalista vasco en este tema ha sorprendido a propios y extraños tanto en el pnv como en bildu porque decir que el gobierno vasco hará otro estudio si se llegan a acuerdos en los criterios eso es mero postureo

porque si no hay acuerdo en los criterios no habrá estudio y continuarán los agravios territoriales

que cada día es más potente tampoco se acepta la demanda socialista de crear un órgano interdepartamental en el gobierno en el que participen aquellos departamentos

con el fin de aprovechar todos los recursos públicos en una oferta turística y conjunta de forma que también se aúnen y coordinen esfuerzos desde el propio gobierno vasco para establecer por ejemplo medidas contra la precariedad laboral y el déficit de profesionalidad que son verdaderas amenazas en el sector turístico y algún motivo inconfesable habrá y que los socialistas

pero la obstinación del gobierno vasco y de este departamento consejera en concreto para no crear órganos consultivos de asesoramiento o de coordinación

porque al no tener la consideración de empresa turística pierde el estatus jurídico actual y no se regula sus relaciones con la administración

cosa que no ocurre con otros sectores similares como por ejemplo el comercio que sí dispone de normativa propia el subsector hostelero de la restauración con esta nueva ley que deroga la de mil novecientos noventa y cuatro se queda sin regulación sobre los principios que van a regir las actuaciones administrativas todo se fía al voluntarismo de un gobierno que en breve estará en funciones y se desconoce cómo van a articularse por ejemplo las ayudas en los presupuestos a este sector al menos representa el cuatro coma cinco por ciento del producto interior bruto en euskadi un sector que se queda como digo sin estatus jurídico sin apoyo legal en su relación con el gobierno vasco y tampoco contempla esta ley

que las viviendas de uso turístico quedaran excluidas de la aplicación del principio de unidad de explotación porque por sus propias características su cumplimiento es inviable y lo saben además

han introducido por su acuerdo el conocimiento y uso de las lenguas oficiales de euskadi como requisito para la clasificación de las empresas turísticas de alojamiento

de la categoría ya solo conociendo aunque sea de lejos las estadísticas de la procedencia del turismo en euskadi se puede entender que este acuerdo

un exceso una injerencia en las relaciones entre privados y vulnera algo que ha sido un principio sacrosanto el que hemos oído de todas estas reuniones de trabajo con la ley un principio importantísimo el consenso con el sector los socialistas no compartimos

porque no ha tenido ni un mínimo debate en la misma porque ha sido un trágala y vamos a pasar al artículo siguiente y el gobierno ha sido y parte en esta jugada y solo él será el responsable ante el sector de sus consecuencias

es el relacionado con los nuevos canales de oferta turística los portales y plataformas de mercados comunitarios que están estableciendo inercias imparables

los socialistas planteamos que se realice un estudio sobre la economía colaborativa en euskadi en materia de alojamientos tomando como base la comunicación de la comisión europea

agenda europea de economía colaborativa con la finalidad ese estudio en el plazo de un año que realizase adaptaciones legales y reglamentarias aquellas que resultasen necesarias con el fin

las empresas y las propias autoridades públicas pudiesemos participar con confianza en la economía colaborativa en el caso de euskadi y se ha vuelto a decir no con la excusa peregrina de que la economía colaborativa abarca más ámbitos que el turístico y que debe ser objeto de un estudio más amplio en fin que no somos capaces de trabajar lo específico y vamos a ser capaces de trabajar lo global por elevación

otra oportunidad perdida para que una ley como esta de respuesta a los problemas de hoy y del futuro más cercano y de sobre todo seguridad a la ciudadanía

en españa y en el mundo y para finalizar este primer turno quisiera agradecer a los y las ponentes a los dieciocho comparecientes que tuvieron a bien venir y asistir a la comisión con sus exposiciones aclaraciones y propuestas también aquellas que se nos hicieron llegar por escrito porque aunque

hemos podido acercarnos conocer y sensibilizarnos ante problemas muy diversos que tienen en su día a día los diversos agentes del sector turístico

institucionales de turismo que acudieron a nuestra convocatoria porque nos hicieron partícipes de las diversas visiones que desde el ámbito político y de la gestión pública

golpe o para castigar al gobierno no le íbamos a dar la patada en el trasero al sector del turismo

y es cierto que ha habido necesidad de acortar los plazos en lo que es la tramitación

para que se haya desarrollado un intenso trabajo de interlocución con los diferentes agentes que componen este sector a través de multitud de reuniones y contactos

parlamentaria porque ha habido que acelerar los plazos pero desde luego esta ley sí que viene arropada

e incorporar la voluntad del sector en el cuerpo de esta ley y eh bildu ha tenido claras dos líneas transversales aparte de las ya mencionadas a la hora de afrontar mejorar en diferentes aspectos de la ley por un lado el euskera nos parece

la incorporación del euskera como requisito en diferentes ámbitos sea objeto de polémica y sea objeto de críticas como lo ha sido con anterioridad y también aquí hoy mismo porque los ciudadanos y ciudadanas vascas que hablan en euskera y que quieren ser atendidos en euskera tanto por la administración como por grandes instituciones que por sus recursos económicos y de personal

tienen derecho a que se les atienda en euskera porque es una lengua oficial de este país

ante medidas concretas de avance en los derechos en las defensa de los derechos de los euskaldunes

en contra a denunciarlo nos parece absolutamente lamentable que a estas alturas estemos todavía así y también hemos introducido aquí nadie ha hablado de obsesiones de eh bildu

la protección de los derechos de las personas trabajadoras en este sector sus necesidades de formación

a la hora de evaluar la calidad de la oferta turística es decir una

que solo eh bildu ha traído aquí aunque hay que decir que ha recogido posteriormente apoyo por parte de otros grupos el euskera y la defensa de los derechos de los trabajadores

que eh bildu ha incorporado a esta ley desde un punto de vista técnico hemos realizado también mejorar que aclaran y evitan posibles ambigüedades que generaban preocupación hemos definido mejor el concepto de establecimiento

tal y como se entiende de forma coloquial del establecimiento de alojamiento para evitar que se pudieran generar consecuencias y obligaciones jurídicas indeseadas hemos clarificado la cuestión

se ha clarificado tanto en el texto como se ha explicado en el debate de la ponencia que simplemente busca la clarificación en las relaciones entre la administración y las empresas turísticas

ningún tipo de consecuencia extraña hemos mejorado el modelo

para clarificarlo y para que las personas que los suscriban tengan perfectamente

sus derecho y sus obligaciones y finalmente

es uno de los elementos centrales de esta ley hemos dado un tratamiento adecuado a la regulación de los alquileres entre particulares tanto de viviendas como de habitaciones

a turistas mediante contraprestación económica no es una actividad que deba ser regulada en la ley de turismo pero evidentemente cumple todos los requisitos tanto para ser consideradas figuras alojativas como para ser

de turismo esto es una actividad dirigida al turismo y esto debe ser regulado en el ámbito de ley pero además por mucho que se diga la ley no plantea ninguna restricción no plantea barreras de entrada inaccesibles plantea que cualquier persona que quiera ofertar su vivienda

de una simple declaración que no es más que un documento fácilmente rellenable y fácilmente presentable ante la administración que no debe ejercer o que no debe realizar ninguna comprobación ni autorización

no hay ninguna barrera de entrada simplemente se dignifica se registra se genera

de aquellas actividades que se están desarrollando en el ámbito del turismo y evidentemente aquí había que articular intereses distintos no sé si contradictorios pero distintos y esta ley lo hace articula los intereses del nuevo sector emergente también del sector de alojamiento tradicional
lo de las personas usuarias y lo de la administración amaitzen joan
bai y otorga la posibilidad que este nuevo sector a pesar de llamamientos o de

no solo esté reconocido sino que tenga plenas garantías y pueda utilizar el hecho de que tiene una cobertura legal especifica incluso como banderín de enganche para dar más oportunidad más seguridad a las personas que demanden este servicio eta

eguerdi on hoy no estamos hablando de un sector menor estamos tratando sobre la legislación de un sector que en el dos mil quince supuso el cinco coma nueve por ciento del pib en euskadi

para llegar en dos mil quince a más de tres millónes sektore honetan

todo el trabajo que se ha venido realizando estos años viene marcado por el plan estratégico de turismo dos mil veinte

y nos hace únicos en mercados competitivos y preferentes todo este trabajo que se ha venido haciendo y que a las cifras me vuelvo a remitir está dando sus frutos requería de una legislación ad

en nuevos modelos de alojamiento la entrada definitiva y casi

de los mercados virtuales nuevos aspectos de carácter medioambiental y de accesibilidad de las personas o la integración de la sostenibilidad al tiempo vinculado con este último aspecto de la sostenibilidad

una definición del turismo que queremos para euskadi un turismo de calidad

sin perder nuestra identidad nuestros valores nuestra cultura o nuestro paisaje

deberán lograr ese turismo sostenido o sostenible moderno y de calidad que estamos buscando

benetako organoa la ley que llegó a este parlamento venía avalada por la mesa de turismo y lo pudimos comprobar

que tuvimos en la ponencia como en otras que no vinieron precisamente porque ya habían adoptado un acuerdo y pretendían no demorar el trámite la ley

mantiene las esencias de aquella que nos trajo la mesa de turismo

tras aprobar y transaccionar un número importante de enmiendas presentadas por todos ellos

y si bien en primera instancia es cierto llegamos a un acuerdo con eh bildu acuerdo que en ningún caso era un blindaje como se llegó a decir y a los hechos me remito en cualquier caso mi agradecimiento al grupo parlamentario y al señor iker casanova por la voluntad de acuerdo

del tiempo hemos trabajado como decía desde nuestro grupo por intentar aproximar la mayor cantidad de enmiendas del resto de grupos

con el grupo popular hay que ser sinceros los acuerdos han sido menores euskadiko turismo mahaiak onartutako proiektuarekiko diogun errespetutik abiatuta

en este sentido yo diría que las discrepancias que aquí se han resaltado son de tono menor aunque se he intentado con ellas convertirlas en frontispicio de una ley

no les correspondía y han quedado ajustadas a su interés y a su relevancia que la tienen pero en ningún caso son ni la clave del turismo en euskadi ni el elemento

se puede intentar aprovechar la elaboración de la ley de turismo para mostrar

un órgano institucional para el reparto de congresos pero ni parece elevar de categoría y llegar a hablar de cohesión territorial cuando hablamos de un sector el de congresos que no resulta tan relevante para este país ni este país

porque no se cree un órgano nuevo cuando ya existe la mesa de turismo para encargarse de este asunto precisamente independientemente de la casuística de cada congreso de motivaciones para llevarlo aquí o allá solo les daré unos números

el gobierno vasco y sus sociedades públicas organizaron un total de ciento cuarenta y nueve congresos el treinta y seis coma dos por ciento en araba

en dos mil trece gipuzkoa fue medalla de oro en el número de congresos en dos mil catorce lo fue araba y en dos mil quince lo fue bizkaia esto es lo que hay respecto a congresos

ni nada que se le parezca saliéndome un momento del tema por cierto cuando hablamos de congresos de qué hablamos de intercambios de información

de plataformas para las ideas o realmente solo los cogemos los exprimimos y los frivolizamos hasta solo quedarnos con su relevancia que no es tanta para el turismo vuelvo a la ley también se puede aprovechar el debate de una ley como la del turismo para mostrar una discrepancia por la no presencia del sector

que son las de alojamiento y mediación cuando el sector de la hostelería sí que ha quedado incluido en las empresas que realizan actividades de interés turístico

la hostelería no es globalmente un sector turístico como tampoco lo es el cultural o el museístico aunque resultan ambas imprescindibles para una estrategia turística realizan actividades de interés turístico pero en sí mismas no son empresas turísticas como son los hoteles los camping o las pensiones de hecho

sectorial que solamente solicitaba la presencia de la hostelería en la ley porque entendía que era un sector que al salir de la ley podría parecer que quedaba desregulada lo que en ningún caso es cierto y así se le explicó

además de existir múltiple legislación sectorial que recoge tanto sus derechos como sus deberes

a un texto que ha respetado lo que la mesa de turismo nos remitió aunque ya lo he citado nuestra discrepancia con el grupo popular ha sido mayor y sin entrar en detalles solo le señala de que tal disenso se ha venido a que nos han traído una propuesta

nosotros solo hemos trabajado con un objetivo además de atender a lo expuesto por la mesa de turismo

se podrá crear un sector turístico de calidad competitivo y que genere empleos de calidad no se puede competir en el turismo desde reglas diferentes que terminen por degradar el empleo y la calidad de la oferta nadie pretende frenar a quien tiene un piso pueda alquilarlo entero por habitaciones por camas o por sofás cama todos le debemos esa libertad pero nadie y esta ley menos

y siempre que obtenga un ingreso por ello en competencia franca con todo el sector turístico no lo cuente o no lo registre porque en ese momento es su responsabilidad frente a todos los demás que le habíamos dotado de la libertad

socialmente justos y de modo que permitan crear empleos de calidad a pesar de discrepancias puntuales o de fondo todo el mundo ha trabajado con el afán de hacerlo lo mejor posible

sí es cierto que la tramitación ha sido rápida para lo que se estila en este parlamento pero ese aspecto no le quita ni un ápice de calidad a esta ley

para hacer nuestro trabajo un trabajo que nos demandaba la mesa de turismo de euskadi el sector turístico vasco para poder avanzar por la senda del crecimiento de la calidad

el resultado hubiera sido el mismo es cuestión de ponerle voluntad trabajo

creo que hemos tejido acuerdos hemos mostrado voluntad de avanzar juntos lo que me empuja de verdad

y hemos servido desde nuestro papel de legisladores a quienes trabajan por el turismo en euskadi

un lugar para visitar pero con esta ley pretendemos avanzar hacía un modelo de turismo similar

que señaló que nuestro destino de viaje no debe ser un lugar sino una nueva manera de ver las cosas hagamos entre todos y todas que euskadi sea eso
una nueva forma de ver las cosas eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna

tanto por la forma en la que se ha tratado como por su contenido y el primer hecho constatable de esta ley es que siendo necesaria ha llegado tarde muy tarde si se llegan a adelantar las elecciones autonómicas como se especuló en su momento

el gobierno vasco ha argumentado de forma tramposa urgencias que el propio gobierno no ha tenido para traer esa ley aquí al parlamento

la intención de los socialistas vascos no ha sido nunca ni desde el primer día

ha sido la de evitar que el gobierno de patadas al sector esa ha sido nuestra intención

veíamos claro que se ha pretendido dar al parlamento un papel irrelevante en este asunto en este proyecto de ley

ni nos merecemos las parlamentarias ni los parlamentarios

hemos sido los socialistas los únicos que hemos solicitado recabar la opinión de los agentes turísticos para mejorar el proyecto del gobierno vasco y gracias a eso

los problemas los graves problemas los importantes problemas y las inquietudes que también traía consigo este proyecto de ley para muchos de los agentes de este sector si no llega a ser porque los socialistas solicitamos comparecencias muchos de los que estábamos en aquella ponencia

de cuales eran los problemas reales por eso agradezco a los dieciocho comparecientes que muchos de ellos soportaron presiones para no asistir a dichas comparecencias y que sin embargo tuvieron la valentía de venir y contarnos su día a día y esta ley partía es verdad con un amplio consenso

respetamos desde el primer día y por eso nos comprometimos con los agentes turísticos con los agentes del sector y con las instituciones con el propio gobierno vasco

un rigor y seriedad que le ha faltado al propio gobierno que estaba más preocupado por traer un número importante de proyectos en su calendario legislativo

una propuesta resolutiva actual valiente y de futuro para el turismo en euskadi y no acabamos de entender ese pacto bildu pnv

allá por el mes de noviembre sabía de antemano que los socialistas no íbamos a presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley y sin embargo dinamita

por el tema del alojamiento y le impone un condicionante que nunca

ni en las alegaciones ni en el trámite de reuniones con los agentes del sector ese condicionante parte del pacto bildu pnv y es de hace unas semanas esto no viene de hace año y pico así que seamos por lo menos responsables y coherentes con lo que planteamos y defendamos los asuntos como debemos de defenderlos porque señor casanova

accusatio manifesta así que apliquémonos el cuento y no acabamos de entender tampoco que los socialistas al menos para los socialistas el turismo siendo un sector estratégico que genera empleo y riqueza hemos entendido no se apreciaban nuestras aportaciones como una traducción en mejoras que podían solventar problemas importantes y así lo hemos sentido señor tellería así lo hemos sentido entendíamos además que hemos pretendido con nuestras aportaciones evitar una inseguridad jurídica que presentaba el proyecto de ley

de que este proyecto tiene una cierta inseguridad jurídica y los socialistas hemos trabajado con rigor y con responsabilidad en este proyecto y nos preocupa y mucho que a partir de ahora

profuso más de docena y media de desarrollos reglamentarios están previstos a través de esta ley y ya no va a participar la cámara vasca ya no vamos a estar los representantes políticos atendiendo las sugerencias de los agentes del sector ahora va a depender de la relación entre un gobierno y los propios agentes

política y estratégica de alcance para el turismo en euskadi porque hemos tenido una ley vigente durante veintidós años

de atender las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos y esa oportunidad por el ir corriendo a trompicones el pasemos de este artículo al siguiente y el no darnos el tiempo suficiente para la reflexión nos van a impedir

y eso debemos de ser conscientes y como decía

recorrido desarrollos reglamentarios para dar plena validez a esta ley y yo lo que deseo en nombre de mi grupo en nombre del grupo de los socialistas vascos

de las suertes en ese desarrollo reglamentario porque del acuerdo reglamentario que tengan ustedes con el gobierno vasco dependerá el devenir del turismo vasco

los socialistas vascos defendemos la normalización del euskera en todos los ámbitos también en el turístico

que un tema que ha estado ausente en todas las alegaciones del sector para el gobierno se convierta de acuerdo político sustancial de última hora de manera que la clasificación de los alojamientos turísticos y el mantenimiento de su categoría dependa sin ningún consenso previo con los agentes del sector dependa del uso de las lenguas oficiales

para eso existe el trámite reglamentario que usted ha reivindicado con tanto énfasis y además con razón

pero ustedes solo hacen piedra de escándalo de la cuestión del euskera me remito a lo dicho anteriormente a la hora de los compromisos concretos sobre euskera ustedes siempre en contra antes hemos tenido oportunidad de escuchar al señor iturrate hacer una encendida declaración casi de amor diría

cercano al éxtasis yo creo que es la única persona de las pocas personas que ha podido apreciar que esta ha sido una legislatura activa yo estoy absolutamente de acuerdo con las críticas que se han hecho

paupérrimo tanto en el número de leyes presentadas como en el contenido político

la falta de actividad y la falta de acción legislativa de este gobierno pero no hagamos que la profecía

que nos traen si esas leyes son buenas para luego poder decir que han hecho pocas leyes si este gobierno va a hacer pocas leyes con ley de turismo o sin ley de turismo entonces no es oponerse a todo por sistema y decir que no a todo hacer oposición es oponerse a aquello que uno cree que debe oponerse pero también dar cauce y dar posibilidad de que salga adelante aquello que cree que supone un beneficio para la sociedad es actuar con responsabilidad es actuar con seriedad y no generar

y que querían esta ley y que la querían ya no trasladarles a ellos nuestros problemas nuestras cuitas entre partidos y no hacer que esas diferencias bloqueen una ley que es necesaria que quieren y demandan esa ha sido la actitud de euskal herria bildu y por eso hemos dado

y yo digo es una oportunidad perdida también para el psoe el habernos presentado aquellos elementos revolucionarios

porque efectivamente usted dice que se pierden oportunidades pero no concreta luego cuáles son esas oportunidades perdidas cuáles son regular la hostelería cuando el ochenta y cinco por ciento de la hostelería está fuera cuando apenas había seis decretos en la anterior ley de turismo que hicieran efecto a la hostelería cuando la hostelería tiene otro tipo de marco regulatorio suficientemente satisfactorio y en todo caso

de tal carácter que exigiría una regulación específica porque está en su inmensa medida en su inmensa medida fuera del ámbito de la ley de turismo cuál es

del turismo vasco de vanguardia crear un órgano interinstitucional para repartir los congresos aquí en el trámite de esta ley hemos obtenido una garantía del gobierno de que se va a abordar el problema

ágil que de forma inmediata pueda responder a esa problemática en este caso en una subcomisión de la mesa del turismo para qué crear una nueva comisión ad hoc para un tema concreto cuando existe un órgano lo importante no es que se cree una comisión sino que se aborde y sobre todo que se resuelva el problema un problema que denunció eh bildu yo en alguna ocasión que el partido nacionalista vasco considera que el ombligo del mundo está en sabin etxea yo entiendo

entiendo que puede existir esa discriminación en torno al número de congresos pero creo que lo importante no es cómo se resuelve el problema sino que realmente el problema se resuelva y nosotros hemos obtenido un compromiso del gobierno vasco para que la mesa del turismo cree una comisión específica para abordar

tampoco hay ningún problema entonces yo no veo cuáles son esos contenidos revolucionarios que podíamos haber incorporado a esta ley y que no se han incorporado porque en realidad

el pp sí que ha hecho una propuesta coherente es decir niega la realidad niega que haya una gigantesca bolsa de economía sumergida niega que la gran mayoría de este sector esté fuera de regulación me refiero a la cuestión de las viviendas de uso turístico y habitaciones alquiladas entre particulares lo niega dice que todo está muy bien que sigan las cosas así que sigan en el ámbito privado no hace falta ningún cambio

pero ustedes no han planteado nada ustedes no han planteado nada de fondo han planteado una serie de mejoras que se han aceptado y otras cuestiones con las que discrepamos políticamente pero que en ningún caso tiene la entidad

un carácter revolucionario o ese salto hacia adelante en el sector del turismo por tanto yo creo que nos encontramos con una ley que es suficiente con una ley que efectivamente nos ha obligado a acelerar los trámites pero dígalo todo también señora corcuera

teníamos que elegir entre hacer el trabajo más intensamente en el ámbito parlamentario y hacer también un trabajo paralelo

de estar con ellos y de conocer también sus aportaciones no significa que se les haya privado de voz pero sabíamos que en estos momentos

no había ley de turismo y que teníamos un vacio de varios años por delante

la mecánica que se volvía a poner de cero por tanto hemos actuado con responsabilidad hemos dado pie a una ley de turismo

a las necesidades del sector y que pueda articular un sector económico dinámico y en crecimiento y en el ámbito de las nuevas formas asimiladas a la economía colaborativa

necesario legítimo y a promocionar pueda tener un marco regulatorio adecuado que no se les imponga ninguna barrera pero que al mismo tiempo dé garantías a la administración y a las personas

total garantía legal por todo me reitero en los agradecimientos anteriormente expresados

a las personas que componen este sector a las cuales creo que hoy les vamos a otorgar un instrumento

mahaiburu andrea eguerdi on berriro creo que voy a ser cualquier caso me quedo con lo dicho me quedó con el sí crítico

lo agradezco eso supone sumar más a esta ley cuanto más sumemos mejor

que no me molesta salvo que me alivia viniendo de quien viene

quién puede acusar a esta ley o a este grupo de alcanfor sino el grupo popular y no tenemos más que mirar

si eso no es alcanfor ya me contaran ustedes pero bueno no voy a entrar a mayores hombre señora corcuera el desarrollo reglamentario las leyes

puedan tener esa agilidad yo no tengo ninguna duda de la relación del gobierno con el sector turístico

hay que dejarle al sector turístico que hable con el gobierno y que elaboren toda esa cantidad de desarrollos reglamentarios

que no elaboran internamente reglamentos y que los derivan la labor del parlamento en cualquier caso también seguirá estando ahí vigilando la elaboración de esos reglamentos no es como que ahora

y respecto al euskera tampoco exageremos

dice reglamentariamente se establecerá la clasificación y dice en todo caso se tendrán en cuenta y considera una serie de cosas

se considerará para hacer un reglamento de clasificación y oiga en euskadi no considerar para clasificar

de los derechos de los consumidores no establecer

lenguas oficiales de la comunidad para considerar la calificación de establecimiento me parece muy fuerte yo creo que no se requiere ningún consenso eso es lo que sale en la ley en cualquier caso insistiré en que le agradecemos el sí aunque sea crítico también ha dicho antes que son los acuerdos que pueden sorprende

pero son acuerdos y una vez alcanzados ya dejan de sorprender y como dice la jota

las loas que nos ha dirigido el señor iturrate a todo el grupo parlamentario que yo agradezco personalmente

mucho de esto es mi última intervención en el pleno agradezco también a todasy a todos cómo me han facilitado el trabajo en esta mi primera legislatura en que empecé muy nervioso y ya poco a poco voy perdiendo y como soy

y he visto una frase que me ha venido pegada al pelo independientemente de que el lehendakari nos deje un verano más o menos largo eso es voluntad de él que para eso está reflexionando entonces

me quedo con la frase de alguien que también hacía leyes hacía leyes pero de química

a veces hacemos alquimia hizo una ley

tenemos que hacer leyes que tienen que funcionar para un universo imperfecto esa es la diferencia y él

no es el caso de momento y la frase que me gusta

que dijo es una pena irse porque esto comienza a ponerse divertido eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna

bereiztea eskatzen da juntos o separados separados

presidenta más allá de que no he podido participar en el debate de esta ley sí que me gustaría realizar algunas consideraciones generales

sobre algunos de los temas tratados el proyecto de ley de turismo pretendía básicamente renovar y adaptar a los nuevos tiempos la ley vasca de turismo de mil novecientos noventa y cuatro

modificación parcial en el año dos mil ocho el proyecto de ley pretendía fundamentalmente dos cosas por un lado adaptarse a la directiva europea sobre liberación de servicios en el mercado interior y por otro regular una nueva realidad turística

turísticos es decir el hecho de que personas alquilen unilateralmente una habitación de su casa normalmente a través de un portal de

arrendamientos urbanos y escapando de los requisitos señalados

la existencia de esta nueva realidad turística ha tenido en armas al sector desde hace meses quien ha venido denunciando una supuesta situación de competencia desleal la ley aborda además un buen número de aspectos fundamentalmente técnicos como es el principio de unidad de explotación

las responsabilidades en los casos de que existan varias personas en la comercialización del alojamiento aspectos relativos al cumplimiento de la legislación medioambiental

de los sujetos y agentes que intervienen en el ámbito turístico si de este proyecto de ley desaparecieran la obviedad de cumplir la legislación existente en otros ámbitos o aspectos que están contemplados en la legislación estatal y que hay que cumplir sí o sí y pequeños matices que se han introducido en determinadas áreas

bastante considero que con este proyecto de ley con esta ley la administración autonómica se atribuye un papel del que ha sido expulsada en parte por el desarrollo de las nuevas tecnologías hoy los grandes retos de la industria turística la primera del mundo se centran

que las administraciones gracias a los nuevos espacios de comercialización en la capacidad de generar y promocionar nuevos productos turísticos que no destinos y en tener la capacidad de articular la opinión de los clientes motivo por el que los viajeros decidimos ir a un lugar o a otro en nuestra opinión la ley nace vieja y no contribuye a impulsar un sector que para competir necesita más oxígeno

o más intervencionismo el segundo dos define el papel de la administración turística la orientación de su política contempla la coordinación y regula las competencias

un comentario el movimiento de viajeros en el mundo está afectado fundamentalmente por aspectos relacionados con la geopolítica en los que nada se puede influir desde una administración regional o nacional o más bien poco por otro lado me pregunto cómo es posible que en una competencia global en la que poco o nada se puede

coordinación y cooperación con una de las marcas turísticas más prestigiosas del mundo como es la marca españa

en materia de política turística que el gobierno determinara cuáles son los recursos turísticos en nuestra opinión

y los viajeros en particular los que articulan qué es un recurso turístico y a dónde ir y por qué por mucho que se empeñe la administración en hacer listas o planes

o disfrutar de un producto turístico en el país vasco o en cualquier parte de españa tripadvisorcom

del gobierno vasco la administración se debería centrar en atender y mantener en buen estado cada recurso destino y de estar atenta a las nuevas demandas o tendencias que se articulan en torno al mercado turístico título relativo a las personas usuarias turísticas no es más que una adaptación de la ley de estatuto de personas consumidoras

en el mercado interior respecto a esta directiva no es necesario señalar que upyd se ha posicionado nítidamente a favor

las disposiciones generales sobre empresas turísticas que son las existentes y no van más allá de las reflejadas en la legislación nacional con algunas incorporaciones menores en el capítulo tres de este título se regulan las empresas turísticas de alojamiento

en viviendas particulares para uso turístico considero que el problema de supuesta competencia desleal ante esta nueva figura que por otro lado siempre ha existido

no se soluciona haciendo que se inscriban en un registro bajo amenaza de multa lo que debe hacer elsector de alojamiento es comercializar bien generar marca y aportar valor añadido creo que eso es lo fundamental tampoco

imponer supuestos derechos lingüísticos que realmente no existen estamos en contra de la pretensión a la simple idea de imponer

de algo absolutamente innecesario existe el derecho evidentemente a expresarse en euskera pero en el ámbito privado no existe ningún derecho a que a uno se le atienda

intento por parte de este gobierno en la idea cualquier intento de vulnerar derechos y en concreto cualquier intento de imponer una determinada lengua en fin creo que se ha perdido una gran oportunidad

de esta ley pero en todo caso como he tratado de expresar creo que se trata de una ley vieja una ley nueva pero que nace realmente vieja no es ambiciosa y por eso me he abstenido por lo demás

un feliz mes de agosto o al menos un feliz fin de semana a la espera

y que carguen pilas la batalla por conseguir una euskadi más justa mejor más igualitaria más cohesionada y más unida al resto de españa
continua al menos por parte de un servidor gracias eskerrik asko maneiro jauna